gracias presidenta el representante de eh bildu

producidas o habidas en este parlamento señores de eh bildu las actitudes vergonzosas son las suyas ustedes son la vergüenza de este parlamento es una vergüenza que ustedes traten de impedir la detención de delincuentes como hicieron ayer

para tratar de impedir que delincuentes una delincuente en concreto fuera detenida es una absoluta vergüenza es una absoluta vergüenza

es una vergüenza que ustedes sigan justificando a eta es una absoluta

que ustedes sin condenar a eta estén presentes en esta cámara es una absoluta vergüenza para la democracia que ustedes sin haber condenado a eta tengan representación en esta cámara es una absoluta vergüenza es una absoluta vergüenza que ustedes sean legales porque no son democráticos es una absoluta vergüenza que pueda haber un partido legal sin haber condenado

su disolución y es una absoluta vergüenza que ustedes sigan justificando a eta y lo hagan desde esta misma

señores representantes de eh bildu es una absoluta vergüenza que ustedes estén presentes en este parlamento sin haber condenado

a más de ochocientos cincuenta personas a ustedes efectivamente se les debería caer la cara de vergüenza efectivamente sería una vergüenza que en esta cámara hubiera parlamentarios que justificaran los malos tratos a mujeres o que defendieran el racismo o la xenofobia

a las mujeres sería una vergüenza y nadie lo aceptaría pues bien ustedes señores de eh bildu siguen justificando las acciones criminales

a la totalidad porque esto no puede permitirlo la legalidad vigente

y por eso pedimos que sea delito negar que hubo crímenes terroristas cometidos

votaremos la enmienda transada entre el grupo popular y el grupo socialista señor lehendakari

y profundamente desolador que usted lehendakari de todos los vascos no vaya a votar la transaccional firmada por el grupo popular y el grupo socialista me parece tremendo que usted se una con su voto

me parece tremendo desolador que nuestro lehendakari

no vaya a decir hoy aquí que en euskadi no hay presos políticos me parece tremendo y profundamente desolador señor lehendakari

que reflexione usted y reflexionen todos los parlamentarios del grupo nacionalistas vascos hay tiempo todavía para que ustedes digan en esta misma tribuna y con su voto que en euskadi

ustedes deben decirlo reflexionen no hay que llevar a ninguna ponencia este asunto es un tema absolutamente básico ustedes tienen que decir que en euskadi no hay presos políticos ustedes no pueden unirse en este asunto a eh bildu ustedes tienen que al resto de demócratas porque ustedes son demócratas y ustedes tienen que decir que en euskadi no hay presos políticos es el momento señor lehendakari sería tremendo y tendríamos un problema muy serio si el lehendakari no dice hoy que en euskadi no hay presos políticos la enmienda transaccional

y es muy sencillo votarla a favor y es lo que yo les pido gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jauna daukazu hitza

vino amnistía internacional a esta casa hace un par de días y dijo que había que cambiar

jaime mayor oreja dijo no son simples reclusos y eso exige un tratamiento político singular señor ares

porque hay otros organismos internacionales que dicen exactamente lo contrario incomunicación

esta misma casa pide la desaparición de la audiencia nacional por se un tribunal de excepción

política penitenciaria de dispersión naciones unidas tribunal europeo de derechos humanos comité prevención de la tortura recientemente

usted nos habla de impunidad usted no habla de impunidad

usted no podrá rescribir la historia señor ares y le cojo la palabra sobre la necesidad de asumir responsabilidades

ha dicho por boca de jesús eguiguren que otegi está en la cárcel por venganza política

le parece que sí a usted señor ares cómo se entiende el hecho de que

si ustedes no asumen un hecho tan simple en el debate de hoy subyace

ustedes deciden de qué se puede hablar en esta cámara y de qué no cuándo cómo y por qué espero que acepten que si hoy esta cámara no apoya a sus posiciones lo interioricen y en el futuro cejen en su empeño abandonen no lo que piensan

sino abandonen la actitud de represalia de coerción la dinámica de criminalización de buscar nuevos elementos para la ilegalización de aquellos

y expresan sus ideas de otra manera gutun bat badaukat urtza alkortarena berak eman zidana beltrán de herediari

llevo más de treinta años defendiendo la democracia luchando por

al terrorismo respetando las reglas de juego y las leyes y cuando no me gustan impulsando medidas para cambiarlas y eso es lo que nos diferencia a usted y a mi porque usted lleva una parte importante de su actividad política haciendo todo lo contrario amparando y justificando las actividades terroristas dando cobertura

de las que usted seguramente tendrá que reflexionar para asumir las responsabilidades de su pasado todos no somos lo mismo en política todos no somos iguales

miren si es que hay cuestiones que se resuelven leyendo algunos de sus dirigentes o responsables institucionales hoy el señor garitano cuando las leyes son injustas un gobernante no debe cumplirlas una curiosa forma de practicar la democracia y el respeto a las leyes dice la próxima semana van a ser otros seis jóvenes en navarra los que sean detenidos y dicen la juventud vasca

y reaccionarán pero dice más dice

es aquel que ha desarrollado su actividad política o en su caso la actividad armada que sería ilegal por razones políticas es una curiosa forma

dejar claro cuál es su posición pero además dice que la sociedad que quiere ser democrática y normalizada no puede tener setecientos o ochocientos presos políticos en la cárcel para poder ser una sociedad normalizada y democrática qué tiene que haber amnistía borrón y cuenta nueva como les decía antes eso es lo que ustedes defienden eso es lo que le están trasladando

ustedes llaman sus presos el engaño porque trasladarles que defienden que va a haber amnistía o soluciones colectivas simplemente es un engaño

ha participado en muchas ocasiones y en todo caso si usted quiere

que dice que no puede haber impunidad para los crímenes de eta sin esclarecer ya ni siquiera dice que no puede haber impunidad para aquellos que han sido condenados

para los crímenes de eta que están por esclarecer porque es evidente que un estado de derecho la policía la justicia los tribunales tienen que perseguir

para que respondan de ellos ante la justicia y

yo he defendido como usted que sobre estas cuestiones deberíamos hacer un esfuerzo para que se trataran en ponencia y buscáramos consensos amplios pero

es evidente que la ponencia de paz y convivencia no está ni el partido popular ni está upyd y por lo tanto tienen todo el derecho lógicamente a traer sus propuestas y sus iniciativas a esta cámara y mientras no se incorporen a la ponencia lógicamente lo harán y

no se puede defender con argumentos el hecho de refugiarse en que estas cuestiones tienen que ir a la ponencia para no pronunciarse sobre cosas tan sencillas como estas

el parlamento vasco considera que desde la recuperación de la democracia

punto uno y lo voy diciendo por puntos porque creo que es importante

el parlamento vasco manifiesta que no existen problemas para defender las ideas políticas siempre que se expresen en el marco de la legalidad y punto tres lo resumo

que no existen presos políticos en euskadi en qué no están de acuerdo

con estos puntos porque por lo tanto si no hay desacuerdo porque es coherente con lo que hemos venido construyendo juntos durante mucho tiempo con la participación de todos ustedes incluido quien es lehendakari hoy de todos los vascos en ponencias parlamentarias

para acordar un mínimo suelo ético y democrático y yo les pido que no lo rompan

adquiriendo con todas las demás fuerzas miren

no verdad y acabo con una cosa se dijo hace ya mucho tiempo quien mata a un hombre

solo mata un hombre y por lo tanto es un asesino permítame

en nombre de los socialistas vascos quiero aprovechar en esta tribuna la oportunidad para despedir

un gran político una muy buena persona es una muy buena persona ha dedicado muchos años de su vida

pero también a buscar acuerdos y consensos

al servicio de los vascos te deseamos suerte esperamos antonio que

sin escoltas esperamos que

que dejas definitivamente la política yo tengo alguna duda porque

te queda como nos queda a otros muchos conseguir lo más importante

llegado este punto yo me pregunto si verdaderamente se ha buscado el consenso sobre

es un preso político o al revés qué significa la definición

o desde un primer momento se han intentado demostrar que existen dos posturas encontradas en este parlamento y que lo que no interesa

de lo que pensamos unos y otros para seguir adelante

no es una cuestión la de hoy que se vaya

no va a ser esa la cuestión hoy se escenificará se votará pero

a poco vamos a llegar se está tratando con beligerancia política algo con lo que no se debería tratar con beligerancia política

por si no ha quedado lo suficientemente claro qué es lo que considera el pnv

de delitos relacionados con la actividad violenta terrorista de eta eta

sus acciones armadas los atentados y asesinatos han tenido y perseguido un efecto político de ahí que sean personas que con objetivos políticos

que desde nuestro punto de vista es un debate que obedece a tiempos pasados y a proyectos fracasados es un debate que en cualquier caso aún estamos a tiempo de pararlo y estamos a tiempo de pararlo no por el interés o para dar

sino porque sino lo hacemos la carga pesará sobre el conjunto de la ciudadanía de este país durante mucho tiempo como trataré de explicar en este momento desde nuestro punto de vista

nos encontramos ante un tren fantasma que se encuentra aparcado en un proyecto en vía muerta esa es la triste realidad del proyecto y por desgracia todavía hoy

absolutamente todo a un proyecto que tiene serias dificultades para ser viable siquiera desde la perspectiva de quienes lo concibieron o diseñaron

a lo largo de esta legislatura el lehendakari en numerosas ocasiones

que probablemente no haya acuñado él pero a la que él ha dado una difusión máxima

esa es la frase con la que de manera reiterada aparece el lehendakari señalando sus propias intervenciones y nosotros nos planteamos

si las personas son lo primero por qué no paramos el tav y por qué no ante esta situación de crisis sistémica en la que vivimos decidimos reinvertir

que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas porque nos encontramos ante una crisis desde nuestro punto de vista civilizatoria que tiene que ver con un carácter materialista y capitalista en la misma que en cualquier caso y en eso y en esta parte voy a decir ahora podríamos estar de acuerdo se ha mantenido desbordando los límites

y ahí es donde tenemos que elegir y es dónde este proyecto nos interroga a todos y a todas nos interpela a todos y a todas para que elijamos o mantenemos un modelo ecológico insostenible

y además lo hacemos pasando de una burbuja a otra por lo tanto retrasando la salida de esta hipotética crisis porque pasaríamos de la burbuja inmobiliaria a la burbuja energética

y la dimensión de gasto que va a traer acarreado el tren de alta velocidad en lo que tiene que ver con la energía con el consumo de energía y sus vinculaciones también con grandes empresas como iberdrola que están haciendo los trazados de alta tensión

esa energía necesaria pueda ser suministrada o aportada y por tanto sigamos elevando esa burbuja o por el contrario hacemos una transición hacia un nuevo modelo ecológico con un progreso real inclusivo para todos y para todas porque nosotros también hablamos de progreso hablamos tanto de progreso que nos resistimos a pensar que el progreso

en la dignidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas porque en esta cámara en este país se ha dicho en más de una ocasión y se ha certificado que el desarrollo sostenible en la comunidad autónoma del país vasco sigue sin lograrse

que no conseguimos lograr los límites de sostenibilidad que nos marcábamos hace dos décadas que nos marcábamos hace una década no lo hemos logrado por diferentes factores y en eso creo yo que podremos estar de acuerdo porque no estar de acuerdo con esta aseveración sería casi no estar de acuerdo con ninguno de los consejeros

u otro han venido a determinar que es cierto que no conseguimos lograr ese modelo de desarrollo sostenible en tanto en cuanto todavía arrastramos herencias del pasado pero

lograr esa sostenibilidad necesaria deberíamos estar de acuerdo en apostar por un nuevo modelo de movilidad sostenible

entra de lleno el tav y nos hablan de progreso y muchas veces cuando nos hablan de progreso nos hacen mirar a europa a europa del norte

o en esta parte de este país en la comunidad autónoma vasca es del dos coma cincuenta y seis en la unión europea en su conjunto del uno coma dos tenemos que progresar más

más del doble por encima que la unión europea a la que miramos como espejo y referencia tenemos que seguir la locura alocada de ser el segundo país del mundo si uno pensara en la clave del estado español por encima de estado unidos

junto o por detrás de japón esa es la dinámica positiva ese es el más progreso que necesitamos nosotros creemos que cuando uno ratios de ocupación tan superiores a los de la unión europea solo caben dos posibilidades que expliquen ese dato uno que hay un mal uso

lo que ya existe o por el contrario que también en esto una vez más

y de enriquecimiento a costa de todos y de todas porque lo que creemos es que se debe analizar el transporte porque de eso se trata y no de otra cosa el tav lo han convertido en icono de la modernidad

es una respuesta a una necesidad de transporte en el caso de que hubiera dicha necesidad pero como digo habría que analizar el transporte en base a necesidades humanas reales y a los limites del territorio y supongo que en esa proclamación en esa frase

también podremos estar de acuerdo ya ven que hoy me estoy abonando yo a las tesis de las bondades del acuerdo pero si es así si estamos de acuerdo

la de dotar a todos los proyectos de una perspectiva o de una memoria ecológica y si lo hacemos veremos que eso no es sostenible

con todos los viaductos con todas las costuras de cemento con toda la devastación de valles con todo lo que ya tenemos encima de nuestro territorio con todo lo que ya está cicatrizando en euskal herria lo dicho en más ocasiones y lo diré ahora siquiera someramente es hora de que cambiemos el chip y tratemos desde otra perspectiva no se trata de economizar la ecología sino de ecologizar la economía de hacerla sostenible de hacerla al servicio de las personas y no para servirse de las mismas y tampoco de nuestro medio natural

y esta rentabilidad social no parece que exista cuando se nos vende las bondades del tren de alta velocidad a la vez que se suprimen cuarenta y ocho líneas de renfe que tienen que ver con las cercanías y las medias distancias o cuando

de las ciento veintisiete existentes cuando se reducen en un treinta y siete por ciento las mismas esa apuesta por el ferrocarril de la que tanto hacen gala no parece

con esos datos y lo es menos cuando desde el ministerio de fomento asumen deudas de las autopistas privadas y esa es la realidad de los socios que este gobierno tiene a la hora de llevar adelante el tren de alta velocidad pero también habría que tener en cuenta la rentabilidad económica la rentabilidad económica

diciendo lo siguiente las redes son importantes pero sin arruinar al contribuyente y nosotros en eso tal vez solo en eso

porque todo el dinero que estamos detrayendo para el tav y no entraré ahora en la pelea quizás en la replica

incluso no solo a través de encomienda de gestión sino a través por ejemplo de los veintiocho millónes directos

al desarrollo de adif y al desarrollo del propio tren de alta velocidad existe

desmesurado e inútil proyecto que están planteando para unir a nafarroa con el tren de alta velocidad y todo esto también habría que hacerlo desde otra perspectiva propuesta la del acuerdo social la del acuerdo social inclusivo

si atender a la ciudadanía es bueno para planificar nuestros municipios para planificar nuestros sistemas de recogida selectiva de residuos o de lo que fuera

por ejemplo a los vecinos de aramayona cuando se manifiestan en contra del tren de alta velocidad

y a día de hoy y puesta muy en duda la viabilidad económica no por nosotros que la hemos puesto siempre en duda sino por diferentes medios de comunicación y por la propia acción del gobierno central a uno no le cabe más que plantearse si ese tren de alta velocidad que ustedes plantean y sostienen y mantienen y así hemos visto en la enmienda transaccional firmada no será si no la mejor plataforma para trasladar ciudadanos y ciudadanas vascas a ese

del empleo llamado eurovegas no sabemos cómo van a plantear ustedes la irresoluble

la y vasca esté finalizada pero se encuentren con que una vez que lleguen a vitoria no haya tramos ferroviarios para llegar

que no nos conectará más que entre nosotros rompiendo así una de sus lógicas de la interglobalidad y la interdependencia que nos iba a conectar y nos iba a abrir las puertas del mundo

pensado en una reflexión sobre un modelo de país que cada vez más se viene abajo por consecuencia de esta crisis sistémica en tanto en cuanto atendía unos modelos de industrialización

que difícilmente hoy se pueden ver como sostenibles o como capaces de mantener a futuro me gustaría que me explicaran

sobre cuándo creen que va a poder estar operativo el tren de alta velocidad que lo digan dos mil dieciocho dos mil veinte dos mil veinticinco pero ojo sin hacernos trampas ese tren de alta velocidad que ustedes decían que nos iba a conectar con madrid y con parís

y también la garantía que iba a desatascar nuestras carreteras de mercancías

que ningún tren de alta velocidad porta mercancías por algo será y obviando también

de la propia infraestructura en kilómetro y año obviando todo eso nos gustaría que nos dijeran cómo van a conseguir conectarnos si va haber un boquete entre burgos y vitoria porque no piensan iniciar las obras hasta que no se terminen las de aquí y los retrasos son más que evidentes porque si son capaces de hacer eso

sino que esté en el lugar de los magos y nos hablan de la rentabilidad económica y nos lo dicen las mismas personas que salen en prensa criticando que el gobierno de españa

que ha exigido que en los tramos que están bajo su tutela directa y efectiva se reduzca la actividad a un quince por ciento para poder así pagar dichas obras

de la finalización cuando debería haber estado culminado en el dos mil once

desarrollado al menos en un cincuenta sesenta por ciento más bien luego ya vendría lo que son las características técnicas de electrificación y demás y se encuentra en un cinco por ciento si los tramos que estaban estimados de terminar para el dos mil trece dos mil doce y dos mil once

qué garantías tienen los ciudadanos de tener una fecha real para poder ver

el tren de alta velocidad hay quien señala a este proyecto y no lo décimos nosotros

bastante partidario del tren de alta velocidad a lo largo de los tiempos cómo

de una lectura de desarrollismo enfermizo y nos gustaría también que hoy aquí se hable de qué va a pasar con los sobrecostes por los retrasos quién los va a pagar me temo que los ciudadanos y las ciudadanas vascas evidentemente estos no vienen estimados pero harán que la obra se encarezca considerablemente

a que coja el tren de alta velocidad si van hacerlo a través de una inyección de dinero público para abaratar el coste de los billetes como ya se ha hecho en otros lugares como se ha hecho en valladolid

como se hizo incluso entre enero y junio del dos mil once en el tramo toledo cuenca albacete

viendo que el transporte de pasajeros equivalía a dieciséis pasajeros al día esa es la viabilidad social esa es la viabilidad económica del tren de alta velocidad pero me quedo con las palabras que ese mismo periódico el lunes

señalaba cuando hablaba de la actual estado del tren de alta velocidad decía que era desolador

y que causaba estupor y aun así hoy presentan una enmienda en la que parece que nada pasara y lo único que entendemos

y nos parece legítimo hagan ustedes lo que quieran el problema es cuando lo que ustedes hacen lo pagamos todos y todas

desde el más absoluto respeto a todos los debates y a todas las iniciativas voy a ser muy breve porque

no repetirse los argumentos y hay veces que es especialmente complicado cuando los debates se reiteran una y otra vez en esta cámara y como pretendo ser

no para el conjunto de los vascos o para los intereses de euskadi sino un mitin destinado a su electorado o a sus acólitos que me parece muy legítimo pero

o donde quiera muy pronto probablemente no tan pronto como nos gustaría a todos los demás pero va a ser una realidad

la alta velocidad en españa en su tramo vasco

y vamos a poder conectarnos con madrid de una manera mucho más rápida mucho más moderna y mucho más eficaz de lo que lamentablemente podemos hacerlo ahora

a través del eje atlántico antes de lo que a usted le gustaría y seguro que más tarde de lo que a los demás nos gustaría pero va a ser una realidad

la menor duda lo hemos dicho en muchas ocasiones el tren de alta velocidad es una infraestructura singular es cierto pero no solo es singular que también por el inmenso

no solo singular por ser la infraestructura pública y privada más importante construida jamás en la historia de euskadi sino que es una infraestructura fundamental porque nos sitúa en el mapa nos sitúa en un eje fundamental para nuestro desarrollo

y para nuestro desarrollo económico porque la alta velocidad no está puesta en cuestión por casi nadie señor matute por casi nadie y es verdad que podríamos estar todos los demás que no formamos parte de ese casi nadie podríamos estar equivocados es verdad que la inmensa mayoría de formaciones políticas podríamos estar equivocadas y ustedes tener la razón es verdad que podría suceder

quiere viajar y quiere un tren de alta velocidad y estar equivocados y estar acertados esa minoría que no quiere puede de ser también podría ser cierto pero lo dudo señor matute

en el resto de países desarrollado y euskadi lo es españa lo es

por el transporte ferroviario y se apuesta además por la alta velocidad se apuesta por una infraestructura ecológica moderna

eh bildu se empeña una y otra vez en que euskadi no se sume

por qué eh bildu se empeña una y otra vez a que no podamos vertebrar nuestro territorio y con él también conectarnos con otros territorios con el resto de europa y con el resto de españa por qué

cada vez más competitivo en el que sus ciudadanos tengan más oportunidades también no solo de transporte sino sus ciudadanos que se dedican al mundo de la empresa

con mejores capacidades y con mejores infraestructuras esa es la pregunta que no va a obtener respuesta estoy absolutamente convencido por lo tanto es una pregunta retórica pero que conviene hacerla votaremos lógicamente

porque dice cosas importantes e interesantes dice que reafirma esto que estoy diciendo que la y vasca es una infraestructura fundamental

estratégica para el desarrollo económico y modernización de nuestra comunidad autónoma

apela a la colaboración interinstitucional y es bueno que herramientas que han dado sus frutos que deben de mejorar seguro pero que han dado sus frutos sigamos utilizándolas insisto en un momento especialmente complicado desde el punto de vista presupuestario

económicos y que además también apelemos a los gobiernos a la posibilidad de ampliar esas fórmulas de colaboración a otros tramos como pueden ser la entrada de las capitales o al nudo

por lo tanto señora presidenta termino ya como se dice cursimente alegrándonos por el acuerdo adoptado y esperando señora consejera

esperando y ahí cuenta con nuestra colaboración y con nuestra complicidad para que el gobierno de españa también impulse dentro de las dificultades presupuestarias existentes esta infraestructura y por qué no

lo antes posible muchas gracias eskerrik asko semper jauna

orain bai mila esker presidente andrea y con su permiso desde el escaño

parece que eh bildu va por el mismo camino nos presenta una moción a consecuencia de interpelación

debates que ya se han tenido en esta cámara la semana pasada fue el debate del puerto de pasajes y hace dos meses

para reiterar el posicionamiento del partido socialista a favor de dichos proyectos y remitir a mis intervenciones en ambos debates

partido popular a la moción que hemos llegado a alcanzar de transacción y simplemente decirle señor matute hay un dicho que dice que una mentira

no por mucho que ustedes presenten iniciativas para decir no al tren de alta velocidad

el tema de las infraestructuras macroinfraestructuras obras u obras faraónicas inversiones productivas o no productivas

ciertamente es un tema interesante ya debatido obviamente en este parlamento

de hecho a continuación vamos a debatir otra vez sobre el trilingüismo el grupo socialista otra vez nos trae el debate sobre el trilingüismo pero en fin no no hay problema por debatir determinados asuntos tantas veces como sea necesario de hecho seguro que este asunto se volverá a traer en el futuro y el asunto del trilingüismo

en el futuro lo cierto es que en este tema nos parece absolutamente fundamental

y para eso creo que hay que hacer un esfuerzo intelectual qué infraestructuras son necesarias y cuáles no cuáles podemos pagar y cuáles no

faraónicas o cuales no lo son cuales son necesarias o cuales son innecesarias en definitiva creo que los políticos en general deberíamos hacer este esfuerzo de ser capaces de discernir cuáles son las obras realmente necesarias y cuáles no

urgentes o cuáles son aquellas que efectivamente pueden esperar en el tiempo porque además es muy fácil echar la vista atrás y comprobar que nos hemos equivocado sobre todo ustedes que son los que han gobernado nos hemos equivocado en bastantes ocasiones tanto es así que en determinados errores

porque no tienen otra solución se trata en todo caso de aprender de los errores para no repetirlos digamos que en nuestra enmienda es un poco mezcla de todo ello pero analicemos primero lo que nos propone eh bildu y el resto en relación a la moción planteada por eh bildu no voy a leerla porque ya la conocen pensamos que los puntos uno y dos de esta moción

de desarrollo de los proyectos constructivos la pregunta a realizar sería qué pretenden ustedes dejar repartidos monumentos al hormigón por todo nuestro territorio

cabe hacerse cuando leemos el punto número uno y el punto número dos de la iniciativa planteada por eh bildu el tercer punto parecería correcto

ya sabemos cómo se ha pretendido históricamente promover los debates sociales

no voy a decir cómo se han intentado promover determinados debates sociales pero todos tenemos en mente cuál ha sido la fórmula empleada por eso que se llama la izquierda

hable de impulsar debates sociales respecto a la enmienda planteada por el grupo popular sería aceptable pero echamos de menos que se introduzca en ella que se hubiera introducido en ella algún tipo de condicionamiento algún tipo de condicionante del tipo que nosotros

defendemos el tren de alta velocidad como infraestructura necesaria pero también proponemos en relación a los tramos guipuzcoanos

a las posibilidades presupuestarias priorizando en todo caso el mantenimiento sin recortes de los servicios públicos esenciales que esto podría haberse señalado y no se recogen ni en la enmienda planteada por el grupo popular ni por la enmienda de transacción respecto a la enmienda del grupo socialista creo que se empeñan en mezclar los hechos casi consumados herencia de otros tiempos en los que no se ha hecho

que las avalara y justificara con la realidad actual en la que a todas luces un proyecto como el puerto exterior de pasajes no tiene en nuestra opinión y ya lo debatimos también ningún tipo de justificación ni medioambiental ni social ni económica en relación a la enmienda planteada por el grupo nacionalistas vascos debemos decir que parece que

replanteando el acceso a vitoria de la línea de alta velocidad pues no lo nombra en el punto número uno de esa enmienda cuando discutamos nuestra proposición no de ley sobre el abandono del proyecto de soterramiento del tren de alta velocidad a su paso por vitoria veremos si ha sido un lapsus o si mantiene lo que decía en los puntos dos y tres

debatiremos en el futuro en concreto cuando proponía instar al ministerio de fomento al gobierno vasco a la diputación foral de álava y al ayuntamiento de vitoria a elaborar un estudio informativo

del tren de alta velocidad en superficie que conecte con las instalaciones del aeropuerto de foronda como modo de potenciar ambas infraestructuras de transporte

por el norte con la línea vitoria bilbao san sebastián o cuando proponía que este parlamento instara a las administraciones anteriormente citadas a que el rediseño de este trazado hablaba de rediseño de este trazado sirva de referencia

y comunicaciones existentes en la ciudad en todo caso ciertamente este asunto lo debatiremos en el futuro

nuestra enmienda de totalidad que en nuestra opinión es la mejor y por eso vamos a defenderla y vamos a votarla finalmente pensamos que es la más razonable ahí está ahí la tienen ustedes no voy a repetirla porque es lo suficientemente

defendemos el tren de alta velocidad como infraestructura necesaria para la mejora de las comunicaciones entre euskadi y el resto de españa y europa instamos al gobierno vasco

a las posibilidades presupuestarias hablamos de introducir la cultura de la eficiencia en los proyectos de inversión y luego instamos al gobierno de españa

financiera de los nuevos proyectos del tren de alta velocidad y los pendientes de licitar

a elaborar un plan de ferrocarriles que promocione con especial atención el ferrocarril convencional impulsando de manera efectiva las conexiones de media distancia y finalmente a elaborar un plan de impulso del trasporte de mercancías en la red ferroviaria española en una red moderna eficaz y competitiva en fin creo que nuestra posición está perfectamente reflejada en esa enmienda la infraestructura del tav

la plantearíamos de otra forma seguramente potenciando antes la mejora del ferrocarril convencional dado que las obras ya se están ejecutando pensamos que sería

la realidad entendemos que esta infraestructura es necesaria para una buena comunicación con el resto de españa y europa pero también entendemos y no podemos olvidar

porque aparte la situación de dificultades presupuestarias lo cierto es que de los tramos y conexiones más allá de los límites de euskadi

además como he dicho dada las limitaciones presupuestarias es mejor plantear o asumir y no creemos que sea ningún drama ciertos retrasos

que no en políticas sociales impulso a la actividad económica o promoción del empleo y salida de la crisis en fin esta es nuestra posición ahí está nuestra

si no es así nosotros también pediríamos la votación por puntos de esa enmienda transaccional que ustedes han firmado

lo primero que debo decirle señor matute es que yo creo que se ha confundido usted de escenario

usted ha hecho referencia ha dicho que este país tiene

la verdad creo que su

al congreso de diputados porque nos propone un debate social que está muy de moda en españa

a las infraestructuras para subrayar el dispendio de recursos públicos

radiales abandonadas como la de madrid como si todas estas actuaciones

pero nada de eso ocurre con la construcción de un eje prioritario que va a unir sur de europa con el norte un eje que debía ser construido hace muchos años señor matute y hay otra cuestión que quiero hacer

a las indicaciones del lehendakari respecto a que primero son las personas antes que otro tipo de inversiones y

deben anteponerse a todo lo demás y buena prueba de ello es el proyecto de presupuestos dos mil doce

al destinado a esta finalidad por otras administraciones en las que gobiernan ustedes

de la moción el proponente justifica la iniciativa en que

criterios que fueron referidos por la consejera en la correspondiente interpelación y que el señor matute nuestro grupo no va

cuanto como ha dicho el señor semper todos estos aspectos ya fueron abordados con motivo

por su grupo y debatida en esta cámara el veintiuno de marzo pasado no han transcurrido ni dos meses de aquello usted decía entonces que era escéptico sobre la posibilidad de obtener una respuesta positiva

y sus pretensiones no tuvieron éxito pero sin embargo usted vuelve a la carga con el asunto sin que aporte razones nuevas o diferentes a las sostenidas entonces basta recordar que la moción que hoy debatimos está firmada por cierto el veintiséis de febrero pasado es decir solicitaba este debate con un plazo

a la fecha en la que se trató esta proposición no de ley en esta misma cámara

como digo no se han producido otros hechos nuevos a razones que inviten a la reflexión o aconsejen un cambio de criterio en nuestra postura y damos por reproducidos aquí íntegramente

argumentos utilizados en aquella discusión

que son las que constan en el expediente administrativo que articula este procedimiento en la plataforma competente para tomar una decisión usted puede acceder a ello sin ningún problema gustosamente tendrá acceso a los mismos y podrá

simplemente decirle que en la evaluación de los proyectos de infraestructuras de transporte se han utilizado

que se puede cuantificar en términos de rentabilidad económica o productiva en términos de empleo o

por el contrario si hiciesemos caso de su iniciativa se producirían dos efectos inmediatos uno

renunciar a la utilización de la obra pública como palanca de crear empleo

y dos que los recursos económicos que ahora se destinan a esta obra se utilizarían por el estado

o sea que haríamos un pésimo negocio en defensa de los intereses de nuestros ciudadanos otro apunte sobre la rentabilidad social

debemos decir que no se trata que no se puede medir solamente del punto de vista económico aunque también la rentabilidad social está directamente ligada a ello pero que es preciso acotarla en el tiempo

la transformación que se ha producido con la línea férrea entre bilbao santander o bilbao madrid hace ciento cincuenta años fue diseñada y construida

de los vascos de aquella época este ferrocarril era como el ave de hoy en día para nosotros sin embargo esta infraestructura diseñada y construida hace ciento cincuenta años hoy en día se ha convertido fundamentalmente

anualmente por millónes de personas aquellas redes se han convertido en prolongaciones del metro de bilbao es decir que hoy en día nos beneficiamos de la rentabilidad social de una infraestructura diseñada y construida hace ciento cincuenta años

sus planes de inspección y por tanto si se produjese

las pertinentes medidas correctoras y finalmente una nota sobre el debate social ustedes tienen la legitimidad tienen todo el derecho del mundo para oponerse a la construcción del denominado tav que por cierto

utiliza estas afirmaciones con mala fe decir que también

cuál es su propuesta sobre el transporte ferroviario en euskadi ustedes no han realizado ninguna propuesta en esta cámara señor matute ni tampoco tienen una sola propuesta al respecto en su programa electoral no sabemos su opinión sobre la conexión ferroviaria entre las tres capitales de la comunidad autónoma

o cómo piensan utilizar el ferrocarril en la articulación del espacio vasco espacio con una importante red de asentamientos y actividades producidas como usted bien conoce

incluido insisto creo de su grupo ustedes simplemente están permanentemente instalados en el no y decir que no ha existido debate

esta infraestructura se halla en la plaza pública de este país que yo recuerde desde el año mil novecientos ochenta y seis

desde hace veintisiete años veintisiete años por eso nuestro grupo considera fundamental la participación de las instituciones y los diversos agentes que puedan tener interés en la configuración de estas infraestructuras

suscribimos en el año dos mil seis la encomienda de gestión para la realización de nuestro gobierno del entramado guipuzcoano de esta infraestructura no obstante estamos preocupados

norte de alta velocidad acumulan un cierto retraso los plazos comprometidos para su finalización no se cumplen por eso proponemos ampliar una fórmula la misma que ya funciona la fórmula en colaboración con otras administraciones en este corredor a su paso por euskadi particularmente proponemos que se encomiende la gestión del nudo

y que ambos gobiernos trabajen conjuntamente con las restantes administraciones afectadas por la

maneiro para decirle que no se incluye gasteiz porque ya existe esta conexión de ahí la explicación de que la problemática gasteiz sea diferente a la de aquí apuntada y se encomiende como digo la gestión de esas actuaciones al estado

señor matute las infraestructuras de transporte ha desempeñado y desempeñan un papel clave en el movimiento de personas y mercancías y tienen por tanto un carácter activo en la configuración del modelo territorial tal y como se ha repetido en numerosas ocasiones a tenor de los documentos de planeamiento desde las directrices de ordenación del territorio hasta el más reciente una de las preocupaciones fundamentales del gobierno vasco

es el mantenimiento de una posición competitiva de euskadi dentro del contexto internacional y en la consecución de este objetivo consideramos fundamental las inversiones eficientes

por lo que desde nuestro grupo no cejaremos en el empeño de dotarnos de estas infraestructuras y en este empeño coincidimos con otros grupos parlamentarios en este caso con el grupo socialistas grupo popular por eso hemos presentado esta enmienda transaccional que

es árido en algunas ocasiones pero le recuerdo lo que he leído por si acaso no lo ha entendido bien

yo he dicho que el índice de ocupación del territorio para infraestructuras en este país es del dos coma cincuenta y seis y lo mantengo

eso es lo que he dicho en cualquier caso para también seguir ahondando en el mayor conocimiento de las posiciones de ambos le vuelvo a aclarar porque ya lo he dicho en comisión en más de una ocasión y lo ha dicho mi grupo en más de una ocasión pero no me importa volverlo a decir nosotros no estamos de acuerdo en la euskal hiria

de los favorables a dicho acuerdo cuando en comisión a la propia consejera y seguramente en el diario de sesiones de esta cámara consta nuestra

que dentro de esa euskal hiria haya un proyecto de malla en red para las tres capitales del territorio que sin embargo aísla a los eskualdes

por la que creemos que el tren de alta velocidad no ayuda en nada

a vertebrar nuestro territorio desde un punto de vista sostenible y responsable

del transporte interno de nuestro país en este caso hablo de euskal herria en tramos cortos no se da en la necesidad de ir a madrid o barcelona que era la gran o el gran elemento de venta para justificar tamaña inversión

que volver a traerlo para volver a dejarlo claro se señalaba por parte del

que este era el proyecto más importante y jamás construido yo eso no se lo niego que este proyecto cuesta cuatro mil millónes de euros sobre el papel es algo que no va a negar el grupo parlamentario de eh bildu digo sobre el papel porque los sobrecostes harán

ahora bien esa justificación de lo más importante jamás construido lo que nos va a situar en el mapa

traen de manera reiterada y probablemente acertada el tema del bec y su sobrecoste

eran las mismas que usted está utilizando hoy para el tren de alta velocidad

la imperiosa necesidad que se esgrimía existía para construir la central nuclear de lemoiz no se construyó no caímos mundo cavernario y seguimos progresando sin embargo es bueno parece ser o necesario para justificar dichos proyectos la justificación tremendista y casi

necesaria de los mismos y sí le puedo contestar si quiere a la pregunta retórica aunque me parece que no le interesa demasiado

tiene más que ver con un recorrido que malle a euskal herria y que nos conecte a través de la velocidad alta y no la alta velocidad que usted sabrá que no es lo mismo porque los radios de acción de la curvatura necesaria es diferente y porque eso hace además

del estado español se está llevando a cabo pese a que en muchos lugares del estado español viene funcionando desde hace mucho tiempo la alta velocidad eso de manera muy resumida porque es el tiempo que tengo es lo que tiene la alta velocidad usted me invitaba a que adquiera más conocimientos

y además gustosamente le pasaría todas las informaciones de las que disponemos para mantener la postura que sostenemos y dos cuestiones muy breves

tampoco me causa urticaria ir a madrid a vallecas me gusta

ver a compañeros como los bukaneros pero no tengo ningún interés en ir a eurovegas porque además si quisiera hacer apuestas absurdas

en muchos bares de este país existen maquinas que me permitirían hacer apuestas absurdas pese a que podría sacar un buen dinero como por ejemplo quién es la persona que menos se prepara los temas o cuál es la persona que viene a esta cámara para hablar de su libro con independencia de cuál sea el tema porque yo seguiré insistiendo con este tema pero le termino con una cuestión

me da igual que sigan empleando la palabra mitin de manera sistemática cada vez que salga al atril yo ya entiendo y seguramente cualquier ciudadano entiende

por cuanto lo intenta situar en niveles de no reflexión yo prefiero que usted siga

a que yo me tenga que ver obligado a pensar que cada vez que sale usted a este atril se piensa que está en el escenario de paramount comedy en cualquier caso señalaré

que es repetir una mentira durante mil veces hasta que se convierta en una verdad pero en cualquier caso no es esa la táctica que empleamos y ya que estamos y finalizo ya por intentar buscar un hilo de continuidad con el anterior debate parece que ninguno de los argumentos esgrimidos les supone

sí les diría al menos que tengan en cuenta este dato que les voy a aportar porque entiendo que visto el debate anterior la sensibilidad

por otra parte es muy elevada en este tema se habla mucho en este país de suelo ético nos llenamos páginas y páginas hablando de suelo ético

nada bueno para edificar nada ni siquiera el tren de alta velocidad que algunas de las empresas

en el pasado hicieran obras para el régimen franquista con batallones de trabajadores o lo que es lo mismo presos políticos del régimen franquista eskerrik asko

aldaiturriaga jauna zurea da hitza sí con su permiso

eserlekutik egingo dut al señor matute decirle que efectivamente repasaré las actas estamos hablando de infraestructura de transporte de tren de alta velocidad usted es que mezcla todo

carreteras en fin yo creo que debía ceñirse un poco al asunto

entonces y reiterarme en que usted ahora de nuevo otra vez sigue mezclando la problemática de euskadi con la de el estado español se ve que ese es su país en fin besterik ez

y el punto por otro lado el dos y el tres el número

presidente andrea legebiltzarkideok el trilingüismo no es un proyecto particular

hacia una educación trilingüe es el mayor reto de la educación vasca hoy en estos momentos

es un proyecto de país una sociedad vasca que queremos trilingüe requiere una educación trilingüe

entre los jóvenes menores de treinta años son la mejor muestra de que nuestro sistema educativo bilingüe

y está dando unos resultados espectaculares son muchos los expertos en cuestiones lingüísticas y educativas

lo que aquí se está haciendo y lo ponen como ejemplo de extensión del conocimiento de una lengua minoritaria todo es mejorable y esto también

nuestro sistema educativo sabemos de algunas de las insuficiencias del sistema de modelos lingüísticos y de alguna de las consecuencias indeseadas

nada de esto puede empañar el notable éxito de nuestro sistema educativo bilingüe del que en mi opinión debemos sentirnos muy satisfechos

no obstante creo que todos somos conscientes señorías de que el bilingüismo se nos ha quedado corto la educación vasca del siglo veintiuno

que ocupa el lugar central en nuestro sistema educativo

una mejora sustancial en el conocimiento de una lengua extranjera principalmente el inglés no será completa nuestra educación para cada uno de los jóvenes que se formen en nuestro sistema educativo ni para nuestro país en su conjunto el lugar

en gran medida en la educación y en la educación trilingüe la competitividad de nuestras empresas en una economía globalizada su acceso a los procesos de internacionalización en marcha nuestro propio futuro en todo lo que significa ciencia investigación e innovación

de un buen conocimiento del inglés entre nuestras generaciones jóvenes a nuestro alrededor señorías nadie está parado

en un mundo globalizado en el que nadie está parado

nuestra posición relativa porque cuando nosotros avanzamos

avanzan y si no lo hacemos nosotros otros van a ocupar nuestro lugar en el concierto internacional así son las cosas

en el que se juega en gran parte nuestro futuro y porque señorías las excesivas cautelas las garantías totales conducen solo a una cosa el inmovilismo nunca se van a dar todas las circunstancias favorables para poner en marcha

nunca ha sido así y tampoco en este caso lo va a ser esperar que semejante conjunciónde astros se dé no nos va a llevar si no a la parálisis total

está suficientemente maduro para dar el paso de un sistema bilingüe a un marco trilingüe sin riesgos ni menoscabo

porque hemos acumulado señorías un bagaje muy valioso en estas tres décadas de implantación generalizada del euskera en nuestro sistema educativo vasco porque nuestros centros están cada vez más preparados en las mejores metodologías

de las mismas y en el aprendizaje integrado de lenguas y contenidos por todo ello creo que ese paso este gran paso

lo que venimos haciendo ahora hace tres años al poner en marcha el marco de educación trilingüe que sobre una base común daba y da una amplia capacidad de decisión a los centros educativos para la elaboración de su propio lienzo de sus propios proyectos lingüísticos trilingües se necesita

y por supuesto voluntad no se pueden de ninguna de las maneras magnificar las dificultades de la implantación del trilingüismo es cierto que europa propone el uno más dos uno en la lengua materna más dos lenguas extranjeras

tenemos dos lenguas oficiales con presencia en nuestra educación y nuestro objetivo ambicioso objetivo debe ser el dos

sino propuestas serias razonables y aplicables para el conjunto del alumnado vasco

o de su nivel socio cultural y por ello es preciso continuar sin menoscabo con el impulso a la formación de los profesionales teniendo siempre en cuenta que efectivamente una implantación de esta naturaleza a de ser paulatina

aprobar una enmienda transaccional entre todos los grupos parlamentarios todas las formaciones políticas representadas en esta cámara

he de decir que yo voy a seguir trabajando para que euskal herria bildu pueda también

a este proyecto que es un proyecto de país porque considero que bildu también a de estar interesada en una generalización del inglés

por tanto a la vez que agradezco a los grupos parlamentarios su disposición para pactar esta proposición no de ley socialista

que voy a continuar vamos a continuar trabajando para poder llegar a un acuerdo de país en relación a la educación trilingüe nada más señorías

gracias el grupo socialista nos trae nuevamente el asunto del trilingüismo que es sin duda un asunto importante que ya

a partir de una moción planteada por el grupo popular los socialistas nos dicen o nos proponen básicamente lo siguiente que la educación vasca

el actual sistema de modelos lingüísticos que la propuesta lingüística requerida por la educación vasca debe ser

de modo que cada una de las tres lenguas sea a su vez objeto e instrumento del proceso de enseñanza y aprendizaje

su actividad educativa y en consecuencia debe conceder una amplia autonomía a los centros escolares para que puedan elaborar su proyecto lingüístico trilingüe y finalmente los socialistas nos proponen que el marco de educación sustituya finalmente al actual sistema de modelos lingüísticos por otro lado el gobierno en alguna interpelación habida ya en esta cámara

a la formación de una ciudadanía bilingüe ni a que el alumnado tenga un conocimiento práctico de las lenguas oficiales a la finalización de la enseñanza obligatoria

proponía avanzar hacia el plurilingüismo desde un bilingüismo real y efectivo con el euskera como eje decía con soluciones realistas y flexibles

señalaba dos tareas fundamentales a realizar el gobierno

por un lado analizar con mayor profundidad la información disponible y concretar un plan de trabajo para el próximo curso que nos permita sacar mayor provecho a este proyecto y el gobierno también nos decía nos dijo en aquella interpelación que este gobierno apuesta

además recientemente la consejera aquí presente dijo que el departamento está estudiando aumentar el número de horas que se dediquen al euskera en el modelo a

en respuesta a una pregunta realizada por upyd el pasado día diez de mayo durante el pleno de control y en referencia al modelo a que el sistema actual basado

no es válido para garantizar un conocimiento práctico de las dos lenguas oficiales nosotros reclamamos que ante el anuncio de la consejera de educación

para aumentar el peso del euskera en el modelo a dicha modificación más allá de que busque una mejor competencia lingüística para todos los alumnos cosa que no está mal no impida ejercer a los alumnos la libertad lingüística ni estudiar en castellano es decir

como que el castellano pueda seguir siendo lengua vehicular para todos aquellos que así lo soliciten la consejera consideró

así la revisión se hablaba de revisión de los modelos lingüísticos en los que al parecer trabaja el gobierno tendría como objetivo conseguir que los alumnos tengan un conocimiento

de ambas lenguas sin embargo no se ha concretado ni de qué manera ni en qué medida se llevará a cabo este aumento del protagonismo del euskera en el modelo a e incluso la propia consejera en una entrevista posterior planteaba el refuerzo del euskera

en todo caso tal objetivo no puede soslayar décimos nosotros derechos constitucionales que deben ser protegidos

justifica la presentación de nuestra enmienda de totalidad y los principios que defendemos cuáles son los principios que nosotros defendemos en este asunto lo que décimos nosotros es sí

y sí a la introducción del inglés sí a la capacitación idiomática de los profesores sí a que se garantice en todo caso que cualquiera de nuestras dos lenguas

puedan ser lenguas vehiculares en la enseñanza puedan seguir siendo en el futuro lenguas vehiculares en la enseñanza y me gustaría por cierto que aprovechando este debate

ellos también están de acuerdo con que cualquiera de nuestras dos lenguas oficiales también en el futuro puedan ser lenguas vehiculares en la enseñanza y

al finalizar la etapa obligatoria una capacitación suficiente en las dos lenguas oficiales euskera y castellano y también en inglés y sí por supuesto que es un principio que siempre hemos defendido a la libertad

plasmado en nuestra enmienda de totalidad finalmente hemos firmado la enmienda transaccional junto con el resto de grupos a pesar de que

lo que nosotros defendíamos en concreto no recoge expresamente

en el punto número dos en todo caso lo debatiremos en breve

pediremos expresamente que esta cámara pida al gobierno vasco que garantice ahora y en el futuro de elección de modelo lingüístico por parte de las familias erradicando cualquier tipo de imposición lingüística y a que garantice tanto en el presente como en el futuro

que cualquiera de nuestras dos lenguas oficiales pueda ser lengua vehicular este debate por lo tanto en concreto este debate lo volveremos a traer a este parlamento y esperamos que reciba tanto apoyo

apoyada por una inmensa mayoría de parlamentarios nosotros traeremos este debate a este parlamento en todo caso yo pido al resto de grupos

con estos dos asuntos que son absolutamente fundamentales para upyd de elección de modelo lingüístico que no haya ningún tipo de imposición ni presión a las familias para que elijan uno u otro y garantía de que el euskera y también el castellano ahora y en el futuro puedan seguir siendo lengua vehicular en la enseñanza me gustaría escuchar al resto de grupos qué opinión
le merecen estos dos asuntos y en concreto al grupo nacionalistas vascos nada más y gracias eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señorías en dos mil diez

a los centros educativos del país vasco sostenidos con fondos públicos

en aquel momento nosotros respaldamos ese impulso del departamento de educación del gobierno vasco se impulsó entonces un programa

en numerosas ocasiones cuando este debate ha llegado a esta cámara en comisión en pleno que iniciaron el primer año cuarenta centros educativos de nuestra comunidad y el siguiente

se trataba entonces de analizar esa experiencia analizar dicha apuesta durante tres años

elevar una propuesta definitiva a esta cámara de lo que tiene que ser en el futuro la propuesta lingüística

la inmensa mayoría de las familias lo hemos reconocido en otras ocasiones la inmensa mayoría de las familias vascas quieren que sus hijos adquieran una

en la enseñanza los últimos datos apuntaban a que más del ochenta por ciento de las familias desean que sus hijos dominen el inglés al termino

se ha convertido se ha dicho hoy aquí se ha convertido en uno de los grandes retos

el inglés se ha convertido en una necesidad básica en una necesidad básica en el mundo de hoy porque sin él todos sabemos que los jóvenes vascos

tendrán limitadas sus oportunidades un joven de hoy que no tenga la oportunidad

tendrá limitadas sus oportunidades de futuro tendrá limitadas sus oportunidades en una sociedad global por eso que todos

los jóvenes vascos puedan acceder hoy a una educación trilingüe una educación que apueste de verdad por el inglés yo creo que tiene que ser un reto claramente impulsado por el gobierno yo creo que ahí en un momento en el que cuando hablamos de educación hablamos de la necesidad de abordar

necesariamente tenemos que pensar que el inglés es un elemento básico cuando hablamos de esos tres conceptos el reto para nosotros del inglés es un reto además especialmente un reto de le escuela pública sabemos perfectamente que además estaremos hablando

en serio de equidad si una escuela pública como la nuestra es capaz de ofertar un proyecto educativo un proyecto lingüístico que garantice a los padres que sus hijos van a poder

si no estaremos cediendo esa posición a la enseñanza concertada que ya está haciendo desde hace años una apuesta muy clara por el inglés los proyectos de trilingüismo están

concertada sabemos además que son proyectos muy demandados por las familias esos centros

superando su oferta educativa la demanda

de esos centros sabemos que eso es algo muy atractivo en este momento para todas las familias y creemos que es necesario que esa sea una apuesta clara de la escuela pública la escuela pública

sabemos además que quien tiene posibilidades económicas aquellas familias que tienen un poder adquisitivo medio alto

pertenecen a un entorno socio económico acomodado tiene las oportunidades fuera de la escuela para que sus hijos aprendan inglés las academias o mandando a sus hijos

pero la mayoría de la población hoy no tiene esas oportunidades ni esas posibilidades y se las tiene que ofertar el gobierno a través de una apuesta clara desde

yo creo que es una posibilidad que ya no tiene marcha atrás que desde luego supone

yo creo que una apuesta que tiene que concernirnos a todos además de voluntad política creemos que necesita y exige

y que eso además requiere dedicar recursos suficientes para su impulso recursos suficientes significa que tenemos que saber analizar

son capaces o no de transmitir conocimiento en inglés

qué programas de formación se necesitan y que otro tipo de programas independiente de la formación necesitamos para fortalecer esa apuesta

de transacción entre los principales grupos de la cámara y upyd todos los grupos excepto eh bildu

también voto de confianza al gobierno para que sepa impulsar el inglés en la enseñanza para que apueste esta vez ya por escrito

una palabra que a todos nos puede unir en este momento esa apuesta por el trilingüismo yo creo que puede ser una apuesta de todos creo que esta legislatura es clave

y como decía hay un acuerdo de todos no se trata de que reproduzcamos aquí otros debates pero sí que nosotros queremos aprovechar lo hacíamos en nuestra enmienda

en nuestra comunidad sin hablar de libertad queremos hacerlo queremos reafirmar nuestro compromiso con la libertad con la libertad de elección con la libertad de las familias

haciendo hincapié en que es posible buscar el equilibrio

analizar los resultados de esos programas experimentales y que nosotros desde luego esperaremos a conocer sus resultados pero que a la vista de esos resultados seguramente

de hacer una propuesta seguramente cabrán varias fórmulas nosotros estamos convencidos de que en este caso es necesario

un cauce central en el que todos podamos encontrarnos yo creo que recuperar consensos lingüísticos yo creo que es absolutamente necesario y pienso que

es compatible con la libertad creo que cualquier fórmula cualquier propuesta tiene que respetar y nosotros os reafirmamos nuestro compromiso con la defensa

el compromiso con que nuestras dos lenguas propias el castellano y el euskera

vehicular de la enseñanza y que además eso pueda ser compatible con una apuesta sincera clara y comprometida con el inglés para que nuestra

sea una escuela competitiva y que pueda de verdad dar confianza en este momento a las familias vascas nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

ez da azkenaldia izango eta ezaguna baino ezagunagoa da gutariko bakoitzaren iritzia a pesar de coincidir con el objetivo inicial el plurilingüismo en el sistema educativo vasco entendemos que el proyecto denominado marco educativo trilingüe tiene algunas deficiencias desde su propio origen

kontrastatu ere además de no contrastar ni acordar el proyecto entendemos que no se basó en ninguna evaluación inicial en relación a cada una de las lenguas no se basó en ningún análisis que determinase la situación que vivían en aquel momento el euskera el castellano y la lengua extranjera

entendemos que no se establecieron unos objetivos a alcanzar en cada una de ellas

dagoela uste dugu nuestro grupo entiende que además de apostar por la enseñanza en inglés en los centros educativos vascos todavía hay margen de mejora también

como del castellano convencidos de ello en nuestra enmienda instábamos al gobierno vasco a seguir impulsando el plurilingüismo

una cuarta lengua decíamos que hacíamos eso con el fin de mejorar la competencia lingüística del alumnado

y proyectos de formación lingüística y didáctico metodológica del profesorado asimismo le instábamos a avanzar los elementos centrales de su propuesta lingüística que sirvan de base para un amplio consenso lingüístico para la educación vasca gaitasun horiek hobetzeko metodologia eta didaktika

recojo el guante señora celaá cuando dice que

con euskal herria bildu y le tengo que decir clarísimamente que si se cree y es cierto lo que hoy ha dicho aquí

va a tener un lugar central y aquello que dijo en la interpelación que le hizo a la señora consejera diciendo el punto clave que condiciona todo el sistema educativo

a todos los centros educativos independientemente de su renta podríamos llegar a un acuerdo y decía

y que ha de ser el punto central de las lenguas en la educación porque es lengua propia y porque solo a nosotros nos corresponde desarrollarla decía usted y decía eta bestetik ere

el trilingüísmo tiene la voluntad de afirmar el euskera como lengua central si es cierto eso que usted está diciendo nik uste dut

lo que permite atribuir al euskera hasta un sesenta por ciento en cualquier centro educativo como es el caso y más de un sesenta por ciento

experimentación no fijó como mínimo el sesenta por ciento para el euskera porque sabe usted perfectamente que nosotros pusimos encima de la mesa un proyecto de aprendizaje y enseñanza de las lenguas el que fijaba un mínimo del sesenta por ciento

que ustedes no lo aceptaron y el pnv tampoco lo aceptó a pesar de que la mayoría de los agentes educativos sí lo veían bien

pnvrena como nos da una de cal y otra de arena pues ya no sé

en nuestro planteamiento en relación a las lenguas de la escuela es

desde un bilingüismo real y efectivo con el euskera como eje con soluciones realistas y flexibles honetan

euskadiko eskola kontseiluak behin baino gehiagotan esan du un modelo que no utilice el euskera como lengua vehicular o lo haga escasamente resulta inviable para alcanzar ninguno de los objetivos propuestos

euskal herria bildu recoge el guante que usted dice vamos a seguir trabajando creo que tenemos un punto de encuentro si realmente

usted cree y quiere llevar adelante que el euskera tiene que ser la lengua central

querrá llevarlo a cabo si nos ponemos de acuerdo ahí creo

podemos ofrecer a la sociedad vasca y al sistema educativo vasco un futuro donde se garantice los niveles competenciales que pide la ley

una de las características del marco de educación trilingüe es se lo digo era el mec plantea un mínimo del veinte por ciento del horario escolar en cada una de las tres lenguas lo que permite su adaptación a diferentes contextos lingüísticos

y lo hace compatible con una dedicación preferente al euskera no es que el euskera sea

es que es es que ya es es que está implantado como tal en la mayoría de los centros por no decir en todos del sistema educativo esa es la práctica desde hace ya muchos muchos años y efectivamente yo realmente creo que daríamos un paso de gigante señorías un paso de gigante

afirmar que el trilingüísmo es el reto contemporáneo que tiene la educación vasca en este momento y que si queremos un país trilingüe

el euskera es nuestra responsabilidad porque es nuestra lengua propia y es propia no porque sea la única

sino porque nadie más la tiene y hemos de saber y hemos de ser muy conscientes que en el sistema en la ley de normalización del uso del euskera

dos son los ejes principales uno garantizar señor maneiro garantizar la libertad de elección de las familias ese es un eje de la ley de normalización del uso del euskera

con distintas leyes que al final de la enseñanza secundaria obligatoria los alumnos las alumnas los jóvenes vascos

esta es otra cuestión importante de nuestro sistema que efectivamente proporcionará cohesión social sí todos ejercemos y ejercitamos estas dos cuestiones en la practica mire yo le quería decir

lo siguiente mire señora berriozabal con respecto a la titulación del profesorado he de decirle

toda la legislación en este momento en nuestro país está dispuesta para que la titulación por la cual se pueda llegar a impartir es decir un maestro pueda llegar a impartir clases en vehiculares es decir vehicular materias

por lo tanto no vamos a hablar de titulaciones escasas porque usted la recordará con toda claridad probablemente a pesar de que

en la contemplación en aquel momento pero usted recordará que nosotros

etcétera no con egas que serian equivalentes a cien uno en el marco de referencia de las lenguas europeas

y podía ser competente para impartir la materia y como nos arreglamos

porque mire usted nosotros tenemos en este momento titulación suficiente e incluso

como para poder generalizar el trilingüismo a nivel de primaria y de enseñanza secundaria obligatoria tenemos justo el doble

por lo tanto tenemos justo el doble si efectivamente la formación del profesorado en inglés continua como se estaba haciendo hasta la fecha y esto no es un lujo esto es una necesidad tendremos y seguiremos teniendo formación del profesorado suficiente

como para poder ir implantando paulatinamente y nunca se hace de golpe naturalmente nadie implantación de un sistema bilingüe a un trilingüe de golpe ni de una cosa a otra de golpe oodremos tener capacidad suficiente colchón suficiente

de la educación vasca y si efectivamente estos señores hacen carretera común y podemos establecer un cauce común

a todos los centros educativos del sistema educativo vasco y le voy a decir otra cosa que tengo escaso tiempo con respecto al acuerdo con respeto a los consensos qué es más científico

un determinado plurilingüismo le llamaban así vagamente a determinadas clases que se daban en inglés en algunos centros los que querían

jamás evaluados jamás modulados es decir por dónde pasa con claridad

nunca en la vida se ha visto cuál era el estatus de cada una de las lenguas oiga el estatus de cada una de las lenguas era el que tenía el modelo a cada una el que tenían en el modelo b cada una y el que tenían en el modelo quinientos cada una

justamente usted cree que no tienen intención y voluntad científica alguien

aquí vamos a ver efectivamente cómo se está comportando el sistema educativo vasco en la concertada en la pública y además no discriminando los centros

origen socio económico de una forma o de otra y esta es la importante para la experimentación el plan piloto viene después

de acuerdo oiga acuerdo completo con toda la concertada ikastolas incluidas y acuerdo con la pública cómo se puede hablar de falta de acuerdo no sé puede hablar de falta de acuerdo al revés pueden ustedes decir que este es el mejor

experimento o experimentación de plan piloto que se ha dado en la historia de la educación vasca nunca eskerrik asko

en cada una de las lenguas ni dónde quería llegar usted al finalizar la fase de experimentación usted nos dirá dónde está la ciencia

ausencia y que en cierto modo nos da la sensación de que se están intentando hacer declaraciones muy redondas

frivolidad seamos serios

para hacer una valoración habrá que valorar los datos que se pueden obtener pero lamentamos que por el hecho de que el gobierno anterior

como sería deseable pero se hará una evaluación y se traerán en base a esas conclusiones una propuesta lingüística que es lo que nosotros pedíamos en nuestra enmienda a la totalidad y lo que está recogido en la transaccional usted nos decía que las garantías totales llevan al inmovilismo

y no lo estaremos pero entre usted y nosotros hay una gran diferencia es que usted actuó por impulso con improvisación y nosotros queremos basarnos en evidencias

el partido nacionalista vasco lleva años diciéndoles que a pesar de estar de acuerdo con el objetivo se estaban ustedes confundiendo en la manera de intentar lograrlo

y también se lo decía gran parte del sector educativo

lo que hay que hacer que casualmente es todo lo que usted no hizo eztabaida hau

que puedan ser la base del nuevo consenso lingüístico que la educación vasca requiere

sustitutoria del actual sistema de modelos por qué se ha quitado eso

andreari erantzunez ya es el núcleo central no no es el núcleo central señora celaá no es

gracias señora presidenta señorías la iniciativa que presentamos desde el grupo popular hace referencia al plan

del cantábrico oriental y cuencas internas del país vasco decir en primer lugar que la directiva marco del agua aprobada por reglamento comunitario en octubre del año dos mil supone una modificación importante de la legislación europea en materia de aguas

de los ecosistemas acuáticos y por otro promover el uso sostenible del agua la base para la aplicación de esta directiva son los planes

que deben elaborarse para cada cuenca hidrográfica y que deben incluir el conjunto de actuaciones necesarias para conseguir los objetivos que marca la propia directiva según el calendario establecido para la implantación

el artículo trece dice que los planes hidrológicos de cuencas se publicarán a más tardar nueve años después de la entrada en vigor de dicha directiva es decir dos mil nueve pues bien el primer plan hidrológico que se publica en el boletín oficial del estado

en septiembre de dos mil once por lo tanto dos años

establece la propia directiva hay que decir que españa cuenta con veinticinco demarcaciones hidrográficas trece de ellas son intracomunitarias es decir están íntegramente comprendidas en territorio de una comunidad autónoma que será la competente para la elaboración de su plan hidrológico de otras nueve la competencia es del ministerio a través de las confederaciones hidrográficas

y tenemos el plan del cantábrico oriental que se elabora de forma conjunta por el ministerio

a través de ura en la parte correspondiente a las cuencas internas del país vasco y se creó para gestionar esto un órgano colegiado de coordinación que integra ambas propuestas decir que durante esta legislatura

hidrológica en españa en la actualidad se han aprobado oficialmente cinco planes

favorable del consejo nacional del agua entre los que se encuentra el plan del cantábrico oriental que serán publicados en breve y se espera que para finales de años todos los planes restantes quedaban veinticuatro

el retraso que españa ha arrastrado en la aplicación de la directiva marco no ha pasado desapercibido para la unión europea así abrió expediente sancionador con condena firme en octubre del dos mil doce y es probable

económica de la sanción no están

no voy a entrar por qué se ha llegado a esta situación

igual tal vez se está informando puntualmente de los avances en la gestión hidrológica y este hecho

hay que reconocer el esfuerzo que el ministerio en esta legislatura catorce meses

como decía el trabajo que ha hecho el ministerio en esta legislatura para que españa se acompase a los demás países europeos en la aplicación de la directiva marco del agua de la unión europea

por qué el plan hidrológico y por qué nos ocupa el plan hidrológico y nos preocupa hay que decir que el plan hidrológico

objetivos medioambientales que consiste en alcanzar el buen estado de los sistemas acuáticos mejora en la garantía de la satisfacción de las demandas de agua

y sequías ese tema que tanto nos preocupa nos ocupa y nos afecta el presupuesto total del plan hidrológico son seiscientos cuarenta y nueve millónes de euros para el período dos mil diez dos mil quince y ochocientos cuarenta millónes para el período dos mil dieciséis dos mil veintiuno

trece años y tenemos siete años

y completar los objetivos ya hemos visto como la unión europea está pendiente de los cumplimientos

de la aplicación de esta directiva y sabemos también y lo hemos visto los métodos que hay un calendario establecido por la propia unión europea para la ejecución de los objetivos y yo creo que hasta el momento lo que está haciendo es controlar los plazos de manera muy ajustada a la programación

programación como les decía marcada hasta el año dos mil veinte que sería el primer ciclo de la gestión

todas las medidas y cumplidos todos los objetivos que afecten a las zonas protegidas dos mil quince que está dentro de año y medio pero además dice la directiva que en el dos mil quince se revisarán y actualizarán

como les decía llevamos un retraso importante los plazos son ajustados y la disponibilidad económica de las administraciones competentes están mermadas por lo tanto la incógnita es qué va a pasar en la revisión del dos mil quince

hay que decir llegaremos a los objetivos marcados para el dos mil veinte las medidas del plan hidrológico que están establecidas hay algunos aspectos que están sin concretar y de ese montante que son casi mil quinientos millónes de euros hay un cuatro por ciento que

está sin determinar quién lo aporta por ejemplo si nos fijamos en las medidas recogidas en el plan y vemos por ejemplo actuaciones del plan hidrológico en materia de inundabilidad dos mil diez dos mil quince que son noventa y ocho millónes de euros

el catorce por ciento las entidades locales están las entidades locales con capacidad

nosotros presentamos esta iniciativa desde un aspecto constructivo nuestra idea es ajustar las medidas a la disponibilidad presupuestaria de las entidades competentes en financiarlas y luego ajustar los tiempos para conseguir los objetivos en los plazos que marca la directiva marco

grupo que apoya al gobierno el grupo de esta cámara nos dice que

los objetivos también entramos a decir que

en la iniciativa con la enmienda de transacción que hemos firmado no obstante sí que hay aspectos que entendemos que se tienen que aclarar por ejemplo

hay un diecinueve por ciento que no tiene definido el mecanismo de financiación y ese es un aspecto que es fundamental cómo se va a hacer si no definimos estamos hablando de un diecinueve por ciento de sesenta y ocho millónes de euros que es una cantidad importante

pues difícilmente vamos a poder ejecutarlas como les decía nuestro grupo presenta una iniciativa

vistas las enmiendas que han presentado el resto de grupos hemos llegado a una enmienda de transacción y

nosotros intentaremos concretar por medio de otras iniciativas parlamentarias estos aspectos que desde nuestro punto de vista quedan

ajustados a la realidad y es la
enmienda de transacción que todos ustedes conocen la que se pondrá a votación nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

erdibideko hori sinatzea y estábamos dispuestos a firmar esa transaccional porque entre otras cosas enmendaba una enmienda originaria

en primer lugar y no solo pero en primer lugar porque pedía que se aprobara un programa de medidas

aprobado y lo pedía en esa propuesta inicial y resulta curioso ver el discurso aquí de la señora lópez de ocariz

la enmienda originaria cuando resulta que es el estado español el que todavía no ha aprobado el plan hidrológico

oriental es el estado español el que no está cumpliendo la directiva europea

en su propuesta inicial al gobierno vasco que apruebe algo que todavía está pendiente de una aprobación que se tiene que dar en el estado español tiene telita

porque la planificación hidrográfica tiene por un lado un programa que ya se aprobó un esquema de temas importantes que ya se aprobaron

es aprobar el proyecto definitivo de plan hidrológico por lo tanto a pesar de que

esos errores de bulto consideramos que la enmienda transaccional viene a enmendarlos nunca mejor dicho y creemos que dentro de la simpleza que tenía en su interior esta se podría

es a pesar de que no hemos podido firmarla como nosotros y nosotras no tenemos ningún complejo votar a favor de esa enmienda transaccional porque más que fijarnos en las siglas nos fijamos en los contenidos y creemos que se puede

con su permiso desde el escaño decir simplemente

para esta enmienda y agradecer a eh bildu a ella esperamos que el parlamentario de upyd también

zioen se elabore en el plazo de seis meses el programa de medidas dos mil diez dos mil quince el plan hidrológico egina ordurako eta

sí gracias señora presidenta brevemente porque me sorprende que se diga que es una barbaridad la iniciativa y luego que es que tenemos que

pues igual en mi iniciativa no está expresada como ustedes interpretan que debería estar expresada pero que hay que darle una vuelta a todo el plan a las medidas a los objetivos y concretar algunos aspectos que están en el aire eso lo sabe todas las administraciones competentes por lo tanto

el buen trabajo que haga sea quien sea porque a mí tampoco me han

que seamos responsables de lo que tenemos entre manos

este plan se consiga depende de la disponibilidad económica de las administraciones y que hay algunas administraciones que no van a poder

a los compromisos que este plan les obliga eso qué nos hace

y revisar cómo vamos a soportar o cómo se va a ejecutar si hay quien no puede responder este plan de medidas está hecho antes de dos mil diez efectivamente la situación no es la misma

español como dice usted no ha aprobado cuándo fue enviado este plan al ministerio usted sabe

de qué habla de qué habla o sea hay una pregunta hecha por

hecha por mí en nombre del grupo parlamentario popular en el año dos mil once y ahí le dirá dónde estaba el plan en ese momento

o sea que lea un poco y luego hable mire la verdad es que

no queremos firmar con ustedes yo he firmado muchas iniciativas en esta cámara con un tal señor

no existe se ha borrado señorías creo que tenemos que recuperar el tiempo perdido

va a requerir de unas aportaciones económicas importantes por parte de las administraciones y que debemos de ser responsables de las obligaciones o los compromisos fundamentales de determinadas administraciones y me estoy refiriendo a las administraciones locales no podemos ahogar competencias propias que tienen esas administraciones y que hay que repensarlo ya veremos

de qué manera va si se va concretando y nuestro trabajo será hacer un seguimiento exhaustivo nada más y muchas gracias

según el último estudio del instituto vasco de evaluación e investigación el maltrato entre iguales en educación primaria y eso

afirma haber visto casos de exclusión continuada de alumnos o alumnas

afectivo sexual los centros educativos son contextos donde se producen aprendizajes a través de relaciones e interacciones

y de género es por ello que son espacios privilegiados para trabajar con todo el alumnado desde una mirada inclusiva democratizadora y ciudadana

el rechazo y las actitudes y conductas hacia las personas que no cumplen con los patrones de género dominantes el parlamento vasco consciente de la capacidad transformadora de la educación

a integrar el enfoque de género y de diversidad sexual en las herramientas de planificación del centro al profesorado y a las familias para que se formen sobre sexualidad género y orientación sexual

activamente ante el sexismo y toda manifestación de homofobia y transfobia horretarako eusko legebiltzarrak manifestu hau aldarrikatzen du